e indubitado desde el primer punto de mi intervención cuál es la actitud de este consejero y del departamento que tiene el honor de dirigir en relación

para que esto no generara dudas en nadie pero veo que hay escrutadores

ni yo como consejero de administración pública y justicia de este gobierno ni el departamento que tengo el honor de dirigir

compartimos suscribimos respaldamos o estamos de acuerdo con la vigente ley de tasas judiciales se

en mi caso además fíjese hay un dato adicional que avala mi posición y es que yo estaba en el congreso de los diputados cuando se tramitó y aprobó esta ley y me posicioné en contra de la misma no en el dictamen porque el dictamen como seguramente no se le ocultará se habló

pero estuve presente no todos los diputados estuvieron pero yo sí estuve presente en la sesión de totalidad en el pleno de totalidad y voté a favor

de todas las enmiendas de devolución que se plantearon en aquella jornada exactamente igual que según creo recordar estaban presentes el hemiciclo

ramón jáuregui odón elorza exactamente igual que ellos

votamos a favorde todas las enmiendas para la totalidad que se presentaron así es que como lo he dicho ya en muchos foros incluido

en mi primera comparecencia en comisión lo vuelvo a repetir sin ningún tipo de inconveniente de cara a que la cuestión quede patente

por qué no estoy de acuerdo con esta ley de tasas mire

no arrancade una posición digamos de principio en contra del establecimiento de tasas que puedan gravar de alguna manera de acceder al poder judicial

diez barra dos mil doce del veinte de noviembre pero no estoy in abstracto y por principio en contra

gravar en algunas circunstancias y condiciones el acceso a la justicia porque todo depende de cómo se pueda configurar la tasa de acceso a la justicia

las tasas se pueden exigir por ejemplo a todo tipo de personas sean físicas o sean jurídicas

a las entidades mercantiles que tengan una facturación anual de doscientos millónes de euros o superior a mí como principio no me parecería mal por ejemplo una tasa establecida para personas jurídicas

solo para el orden jurisdiccional civil también para el contencioso administrativa o también para el social

a la tasas se le puede poner una tarifa muy diferente alguna razonable y otra absolutamente desproporcionada por lo tanto no todas las tasas imaginables

para este consejero así lo ha dicho también el tribunal constitucional así lo ha dicho también el tribunal europeo de derechos humanos

diciendo que siendo en principio legítimas las tasas de acceso al poder judicial o a la justicia

cuando su cuantía las convierta en un obstáculo impeditivo para el acceso a la justicia no es una posición original

es exactamente la misma que cincuenta diputados socialistas han expresado en dos recursos de inconstitucionalidad que se han presentado la primera contra la ley

veinte de noviembre del dos mil doce y la segunda contra el real decreto ley tres barra dos mil trece que modula algunos contenidos

recuerda usted en su interpelación el foro social y retoma el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad contra cualquiera de las dos

la ley de veinte de noviembre del dos mil doce o el real decreto ley de veintidós de febrero de dos mil trece

no sé yo no seré yo quien me oponga a la reivindicación del foro social vasco

que promueva un recurso de inconstitucionalidad supongo que ya no contra la primera ley porque estaríamos fuera de plazo pero sí contra el real decreto ley

pero sí le recuerdo que efectivamente esta cuestión fue planteada aquí en debate y no recuerdo que el partido socialista fuera

sí sí eh bildu sí lo planteó en mi primera comparecencia en comisión y después

pero el grupo socialista no tenía ningún interés puede resultar llamativo que eh bildu mostrara digamos aquella fe ciega en el tribunal constitucional ahora que han obtenido resoluciones

puede resultar llamativo sorprendente chocante e incluso paradójico el hecho de que

entregados a la objetividad a la imparcialidad del tribunal constitucional pero lo cierto es que el único grupo parlamentario que aquí ha planteado formalmente

el partido socialista no fue beligerante en ningún momento es más es más la enmienda transaccional

en ese pleno al que se ha referido usted del treinta y uno de enero del año dos mil doce no incorporó nada

en función del pronunciamiento del foro social me parece muy bien y es legítimo

de veintidós de octubre a instancias de este parlamento ya nos gustaría a nosotros tener influencia suficiente como para que el gobierno central con mayoría absoluta atendiera a nuestras consideraciones no no lo hizo básicamente porque había una recomendación clara

entró en vigor y está desplegando todos sus efectos nos guste o no nos guste y esta ley

dice claramente que se establece una vinculación entre la recaudación procedente de las tasas judiciales y la financiación de la justicia gratuita no es

yo no apoyé la ley en el congreso de los diputados que se aprobó pero no estamos ahora hablando de si la ley nos gusta o no

estamos hablando por tanto desde un panorama del eje data la ley dice lo que dice por tanto usted me dice es que el gobierno vasco ahora

parece reclamar la parte que le corresponde de las tasas judiciales para financiar la justicia gratuita claro que sí es que lo sorprendente es que alguien en esta cámara esté pretendiendo que el gobierno vasco

o se financia aunque sea parcialmente con esas tasas judiciales que vuelven a euskadi o se financian a través de las contribuciones generales de los ciudadanos vascos que pagan mediante sus impuestos para el sostenimiento de los gastos públicos usted no está de acuerdo con esto me sorprende porque le puedo asegurar una cosa mire

multilaterales que se constituyen en el ámbito de la justicia conjuntamente con el ministerio hay dos gobernadas por socialistas asturias y andalucía las dos plantean lo mismo las dos es posible que los socialistas vascos sean una excepción en el globo es posible pero las dos

la ley en su artículo once establece esta vinculación y dice que el resultado

de la tasa judicial de la recaudación de las tasas judiciales se destinará a la financiación de la justicia gratuita

de ser demagógico en este planteamiento no entro en esa consideración porque no interesa a los efectos que

pero que los gobiernos autonómicos socialistas que tienen competencias en el ámbito de la justicia y transferencias realizadas están actuando exactamente igual que el gobierno vasco y reclamando eso es lo que pido lo que me extraña es que pueda haber un grupo en esta cámara que diga que no

sostener con sus impuestos el gasto de la justicia gratuita renunciando a la posibilidad de que la recaudación de esas tasas pueda proceder y por tanto que las tasas se queden en madrid

que pueda haber un grupo parlamentario que plantea que renuncia a esos recursos no puedo entender su planteamiento

vamos a hablar con seriedad no me puede decir usted a mí que

que de la misma manera que la ley de tasas despliega todos sus efectos jurídicos desde su aprobación y entrada en vigor lo hace cualquier otra ley y sin embargo en el gobierno vasco sí decide a veces presentar recurso de inconstitucionalidad en este caso no le estoy diciendo además

inconstitucionales o son aquellas que limitan

y usted usted que es el consejero de justicia dice las tasas ya impiden el acceso a los juzgados a las familias más pobres a qué se tiene que dedicar consejero a constatar un hecho o a buscar soluciones

es que con independencia de que nosotros podamos recaudar lo que nos corresponde podamos estar de acuerdo o no

como otra serie de derechos se pagan vía impuestos vía impuestos

es que si efectivamente usted constata que se están perjudicando los derechos de los vascos para acceder a un derecho fundamental

tenga en sus manos la posibilidad de poner remedio a esa situación

absolutamente clara de cuál era la razón por la que nosotros confiamos en que el gobierno iba a ser

de suplir la inacción del gobierno es más eso es un voto de confianza de esta cámara para que usted consejero y su gobierno se pongan las pilas y actúe en defensa de los derechos de los ciudadanos vascos

de lo que le estamos hablando es de una situación de hecho y de derecho perjudicada

no sé que parte de esto es una sesión de control al gobierno no ha entendido usted señor consejero

de considerar y manifestar en esta cámara qué es lo que a nuestro juicio consideramos que el gobierno nuestro gobierno porque usted es mi gobierno también tiene que hacer en relación con la defensa de los derechos de los ciudadanos vascos

yo no estoy hablando de eso yo le estoy diciendo simplemente que lo que creo que tenemos que hace es defender los derechos de la ciudadanía vasca usted sabe bien que el partido al que yo pertenezco al grupo parlamentario al que yo pertenezco se ha comprometido en buscar acuerdos con ustedes

para resolver los problemas que tienen los ciudadanos los problemas concretos de personas concretas sabe usted de ese compromiso para todo esto que le estoy citando conocemos todas las dificultades económicas conocemos las capacidades reducidas de

captar ingresos para subvenir los gastos lo conocemos consejero conocemos todas esas dificultades de buscar nuevamente de esas fuentes de ingresos y sabes usted que vamos a esforzarnos en

posible saben que queremos hacerlo a través de una fiscalidad más justa más progresiva de una reducción de

institucional evitando duplicidades todas estas cosas que tantas veces los socialistas hemos dicho

y saben también que los recursos disponibles los queremos buscar en empujar la actividad

saben que no nos van a encontrar en la limitación de derechos que no nos van a encontrar en el copago de los servicios públicos que no nos van a encontrar en el pago de tasas que limitan derechos

y saben que los van a encontrar solamente en políticas públicas que garanticen derechos esenciales y que tengan que ser financiados con recursos públicos

consejero la que nosotros queremos es un sistema tributario

sostener todos esos servicios que tantos años y tanto esfuerzo nos han costado conseguir y se están diluyendo como quien explota una pompa de jabón y esto no puede ser por eso por eso

lo que le pedimos fundamentalmente es que se olviden de esas tartas que son

y hambre para mañana y además muchas veces resultan indigestas porque provocan el efecto contrario de lo que se pretende y por eso por eso consejero le estamos planteando que estudie la posibilidad de

empieza su intervención esta última diciéndome que no es esa la cuestión que la cuestión no es si las tasas las tenemos que dejar en madrid o no por favor no me diga que no es esa la cuestión porque es que la ley está en vigor

los secretarios judiciales están llevando acabo su labor ya y recaudando las tasas judiciales la recaudación está siendo objeto ya de un tratamiento estadístico por parte de la agencia tributaria del estado que la recauda

los cuatro primeros meses del año por tanto esto está siendo una realidad a partir de ahí

como hacen los andaluces y los asturianos el artículo once de la ley de tasa judiciales y por tanto pedimos

o les décimos a los ciudadanos vascos a los contribuyentes con carácter general mire nosotros podríamos atenuar su contribución para el sostenimiento de la justicia gratuita pidiendo esas tasas judiciales pero no lo vamos a hacer dejamos que el dinero se lo queden en madrid yo creo que esa es la cuestión

hombre lo que ha hecho este gobierno el gobierno anterior y el gobierno socialista en los últimos siete años

perfectamente el gobierno anterior mire la ley de la que estamos hablando es del veinte de noviembre nuestro gobierno se constituyó un mes más tarde tenían tiempo para poner un recurso de inconstitucionalidad no lo hicieron

nacido un fervor impugnador en relación con esta ley porque hay que ofrecer un perfil

pero lo que ha hecho este gobierno el anterior y el gobierno socialista de zapatero durante los siete años en los que estuvo al frente

me lo conozco perfectamente claro que lo sé entre otras cosas por ejemplo

depósitos judiciales para recurrir que no estaban con anterioridad y se decía expresamente que eran para disuadir al ciudadano

se decía ya en la exposición de motivos de aquella disposición que lo que se recaudase de los depósitos judiciales se iba a repartir entre el gobierno central el estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia en el año dos mil nueve hicieron algo de esto ustedes en su gobierno hasta el dos mil once porque había posibilidad ya estaba recogido en la propia ley de zapatero del año dos mil nueve la posibilidad

para que el impacto de las tasas judiciales en el justiciable vasco en el ciudadano vasco en su derecho a acceder al juez

solo se me ocurren dos posibilidades que no creo que le gusten a su grupo parlamentario la primera es montar un poder judicial vasco independiente cuya administración de justicia no esté subordinada al pago de tasa alguna

sin pagar tasa alguna con un poder judicial vasco independiente pero seguro que no le gusta esta posibilidad

la otra que se me ocurre es que el gobierno vasco se dedique a subvencionar a los ciudadanos vascos

el ejecutivo vasco puedan afrontar las tasas judiciales y presentar demandas y recursos ante el poder judicial competente seguro que esto tampoco

una aberración sería como establecer un cupo paralelo a través de las tasas judiciales para que

una vía tan curiosa tan original como la de otorgar ayudas y subvenciones a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan afrontar las tasas judiciales establecidas por el estado yo estoy tan en desacuerdo con las tasas como usted estoy tan en desacuerdo con el impacto negativo que produce en el derecho de acceso a la justicia como usted o más yo creo que las tomas de posición han sido claras inequívocas y contundentes ahora bien cómo neutralizamos la aplicación de una ley estatal aquí

y se hace operativa a través de mecanismos organizativos que dependen directamente del propio ejecutivo español

montando un poder judicial alternativo no es de su gusto verdad de la otra manera subvencionando a los ciudadanos vascos para que puedan pagar las tasas judiciales sería otra aberración

a cualquiera de estas dos opciones que creo que ninguna de las dos le va a gustar a su grupo parlamentario y creo que tampoco a usted si se le ocurren más ideas estoy dispuesto a escucharlas en serio

y además desde la perspectiva que yo comparto con usted

y hay que garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

buenos días señora consejera durante los últimos días se han producido diversas manifestaciones en torno a la denominada tasa

a un determinado territorio usted ha dicho que de momento no se va a imponer esta tasa pero a la vez reconoce que ha mantenido contactos con cataluña

una contradicción por otro lado los responsables de la diputación

y que lo harán independientemente de lo que decida el gobierno vasco así lo dijeron no obstante también es verdad que anteayer vinieron a corregir al menos parcialmente esta opinión nosotros le interpelamos por las intenciones que tiene el gobierno vasco respecto a la implantación de la tasa turística en euskadi obviamente he escuchado su respuesta a la

socialista efectivamente usted insiste en que la implantación de esta tasa turística no está en su agenda y no lo contempla sin embargo usted sí que ha reconocido que han estado estudiando o que están estudiando esta posibilidad a nosotros nos parece una contradicción cuando hay un gobierno que destina tiempo y recursos a estudiar la posible implantación en este caso de una tasa turística obviamente no se puede decir que la posible implantación de esa tasa turística no está en su agenda es decir cuando está

qué posibilidades existen o cómo le ha ido esto obviamente quiere decir que este gobierno sí tiene en la agenda la posible implantación

ustedes han dedicado tiempo y recursos por lo tanto sí que parece que efectivamente está en la agenda se plantean al menos esta posibilidad bien el motivo de esta interpelación es aclarar todo esto aunque ya digo que he escuchado su respuesta a una pregunta anterior pero me siguen surgiendo determinadas dudas

usted ha dicho que efectivamente no sería en ningún caso una competencia foral

pero es curioso porque la portavoz del gobierno foral esto no lo sabe

tiene claro que efectivamente es una competencia foral

preguntas para que usted pueda responderlas y aclare algunas cuestiones que hayan podido quedar quizás en duda ustedes han mantenido contactos con la generalitat de catalunya bien háblenos usted

antes en la pregunta lógicamente quizás no haya tenido tiempo ahora en la interpelación quizás pueda

cómo han sido esos contactos si han sacado ya conclusiones qué conclusiones han sacado si estas conclusiones son definitivas

está evaluando la tasa para tener datos que avalen la desincentivación que parece ha producido la medida o puede producir

tienen ya estos datos que avalen esa desincentivación se puede considerar que la aplicación de esta tasa tiene un efecto desincentivador

y a la vez seguir estudiando el asunto

usted tiene claro que esta tasa produciría un efecto desincentivador y a pesar de eso o no va a seguir estudiando el asunto su decisión es definitiva o no descarta en imponer la tasa en un futuro quizás esta sea la pregunta

está definitivamente descartada o no descartan imponerla en un futuro y condiciona su aplicación a que no sea desincentivadora

estas son las preguntas que yo le quiero plantear aunque ya digo que

respuesta anterior por otro lado efectivamente en esa respuesta usted hablaba de homogeneización usted hablaba de superar diferencias territoriales

es bastante de upyd quiero decir esto de acabar con las diferencias territoriales entre los diferentes territorios históricos homogeneización en las tasas en los impuestos es bastante de upyd igual usted se está haciendo de upyd yo creo en todo caso que para

acabar con las diferencias territoriales entre los diferentes territorios históricos la vía más directa que tienen ustedes es la reforma de la ley de territorios históricos

de la tasa turística cuya competencia correspondería efectivamente al gobierno vasco pero sí por ejemplo en la fiscalidad ya digo para acabar con esas diferencias territoriales que usted ahora

y o otro paso interesante sería que las competencias fiscales por lo tanto fueran trasladadas a este parlamento insisto para acabar con las diferencias

o diferencias territoriales en fin estas son las preguntas que yo le planteo para que nos pueda aclarar mejor la cuestión ya que en la interpelación pues usted

pero desde luego el comienzo de la intervención no puedo hacer nada más que reiterar lo que ya he dicho en respuesta a la pregunta del grupo socialista y como usted se ha interesado que me reitere y lo explique mejor pues me reitero el gobierno vasco no contempla ni tiene en su agenda

es un impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos de euskadi por ello quizá la portavoz foral de gipuzkoa

porque lo llamamos tasa cuando es un impuesto una tasa es

que poner en marcha luego la competencia claramente es del gobierno vasco y como comentaba hacia el final no tengo ninguna intención de hacerme de upyd

desde este gobierno y desde gobiernos forales en los que ha estado mi grupo el grupo nacionalista y es que los impuestos pretendemos que estén armonizados en todos los territorios y eso siempre

lo hemos dicho en este caso usted hablaba

de la interpelación y también lo ha comentando después que parece que existe una contradicción entre la postura de no tenerlo en la agenda y no irlo a implantar y sin embargo estar estudiando el tema

entre instituciones públicas colaboración público privada con distintos agentes desde luego siendo uno de los ejes de actuación del departamento hemos mantenido diversas reuniones a todos

y también el tema del turismo lo estamos trabajando a fondo hemos estado con distintas instituciones públicas diputaciones ayuntamientos asociaciones de hostelería alojamientos turísticos desde luego para conocer cuál es su situación no solo en este tema porque es un tema que

en las agendas de otras instituciones y para hablar del tema evidentemente

estos agentes recabar información contrastar y conocer sus opiniones el impuesto turístico sin duda es uno de los temas por el que nos hemos interesado especialmente por ser el turismo uno de los sectores en los que en este momento se está produciendo un incremento de actividad y una aportación

económico por el cual nos hemos interesado de forma específica y fruto de ese interés y paso a responderle en qué ámbito nos hemos reunido con las instituciones catalanas

nos hemos dirigido a la dirección de turismo de cataluña especialmente con objeto y en el contexto de nuestra próxima visita a barcelona la semana que viene

de promoción turística de euskadi como ustedes conocerán sin duda que el fin de semana que viene los días catorce quince y dieciséis llevaremos con objeto

de la liga act de traineras que este año comienza precisamente en esas aguas del mediterráneo en ese contexto hemos celebrado esa primera reunión qué datos hemos recabado inicialmente no hay más que una recabación de datos iniciales y estamos procesándolos luego

ninguna aportación más que los datos que tenemos en este momento los procesaremos y sin duda se los comentaré cuando los tenga

y por poner unos datos el año dos mil doce recibió catorce

un dato que representa el veinticinco por ciento del total de entradas turísticas en el estado en dos mil doce y siguen en aumento este número de turistas el gasto de esos turistas internacionales en cataluña fue de doce

de euros luego unas cantidades nada desdeñables desde esa posición considerando

para mantener a cataluña como destino de competitividad y de calidad

utilizar esos recursos como usted sin duda sabe para mejorar la situación de ese sector turístico para financiar políticas de promoción para preservar y desarrollar infraestructuras y demás visto en frío sin más datos que esos parece un dato interesante sin embargo desde luego se trata de un impuesto que recaudan establecimientos hoteleros

sin la consecución de su participación de su beneplácito

vamos a decir de una colaboración entre todos los agentes es imposible de poner en marcha y no sería ni adecuado

muy joven comparando con cataluña datos del mismo año dos mil doce ellos el veinticinco por ciento de las entradas del estado nosotros un dos coma tres con un uno coma tres millónes de personas

ellos doce millónes y medio de euros nosotros setecientos treinta y dos millónes de euros en el primer cuatrimestre de dos mil trece ha disminuido ligeramente

unos datos muy distintos con un aumento del doce coma dos y marzo casualmente ha sido el mejor marzo de los últimos cuatro años son datos que vamos teniendo encima de la mesa creemos que siendo un destino turístico joven como décimos euskadi todavía no se debe plantear en estos momentos el introducir una tasa turística de estas características

el turismo estatal y atraer un mayor número de turistas extranjeros

nos dirigimos hablar además con todos los implicados y no poner en marcha nunca una medida de este tipo

pero por ello precisamente hay que analizar muy bien cómo lo han hecho

para poder saber realmente las consecuencias de una actuación de este tipo las dudas que se pueden plantear en este momento son muchas y eso es precisamente lo que queremos tener muy claro

sobre todo y ante todo ningún afán recaudador nos mueve

queremos trabajar con el sector turístico y hotelero que en este momento además lo está pasando muy mal está sufriendo mucho si no es

en el aspecto en la introducción de este tipo de impuesto siempre vamos a contar con este sector

que ellos no contemplen y que realmente sea en este momento desincentivador fruto precisamente de que somos un destino muy joven y que todavía tenemos mucho trabajo por hacer

y por ello le reitero que a pesar de estudiarlo en profundidad y valorarlo muy bien con el sector con quien estamos trabajando no contemplamos en ningún momento poner

en funcionamiento en esta legislatura pero sí queremos trabajarlo y conocer muy bien qué está ocurriendo en otros ámbitos porque como gobierno necesitamos saber

no solamente en el sector turísticos sino como también lo hacemos en políticas industriales en políticas de innovación o en políticas agrarias también en turismo y comercio necesitamos saber qué hacen otros para poder analizar muy bien esas prácticas

no tan bueno sino algo más perjudicial para todas las personas y todos los sectores económicos de euskadi eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

respuesta ciertamente es un asunto interesante

las respuestas que usted ha dado pero en todo caso este asunto está en la agenda del gobierno vasco

se han interesado por él han recabado información quiere decir que está en la agenda del gobierno vasco o ha estado en la agenda de este gobierno vasco la posible implantación

de esta tasa si no lógicamente no pierden el tiempo informándose sobre el asunto que yo no digo que ustedes no tengan que informarse

y sobre todos los asuntos que sean interesantes para los ciudadanos pero esto obviamente quiere decir que ha estado o que está en su agenda no pasa nada por reconocerlo en todo caso descarta definitivamente la implantación de esta tasa también en el futuro en ningún caso la implantaría si el sector no esta de acuerdo digo por aclarar cuestiones aunque reconozco que usted ha respondido a todo esto pero es por aclarar si descarta definitivamente no solo ahora sino también en el futuro

su aplicación en el caso de que el sector no estuviera de acuerdo

dice que están procesando los datos y ha dicho que todavía no tienen una decisión tomada y

ningún tipo de decisión hay que estudiar los datos por eso digo si quizás más adelante en próximos años el próximo año en los próximos meses

de esta tasa por otro lado ya decía que el diputado general de gipuzkoa defendió la aplicación de la tasa turística del impuesto aunque anteayer la portavoz del gobierno foral dijo que no sabía de quién era la competencia

intentar aplicar la tasa turística o descarta absolutamente esta posibilidad y por otro lado usted decía que

no sería la recaudación qué objetivo entonces tendría la modernización quizás del sector puede ser en todo caso si lo que ustedes plantean es la aplicación de esta tasa quizás en el futuro para tener más ingresos puesto que efectivamente tenemos problemas en la recaudación

otras vías para mejorar la recaudación yo le digo que hay otras vías que hay otras posibilidades en lugar de implantar esta tasa turística por un lado una reforma fiscal a fondo por otro lado luchar más y mejor contra el fraude fiscal por esas dos vías podríamos conseguir

pero es que además hay otras vías también o hay vías para reducir gastos que es tan importante o más que incrementar los ingresos

racionalización del sector público empresarial a través de la modernización y actualización del entramado institucional incluida la modificación de la ley de territorios históricos

gasto superfluo que sigue existiendo en euskadi esto es lo que debería hacer el gobierno vasco antes que plantearse la aplicación

en todo caso en fin ahí quedan algunas otras preguntas que yo le he planteado y en todo caso muchas gracias por su respuesta eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko

señor maneiro creo que le he respondido en la primera pero bueno me voy a intentar explicar todavía mejor

lo que le afecta está en nuestra agenda sin ninguna duda la implantación

impuesto no está en nuestra agenda quiero aclararlo

vamos a analizar y sigo reafirmándome también

en qué condiciones cuál ha sido la repercusión cómo ha respondido el sector y con ello elaboraremos un informe que nos permitirá conocer muy bien qué es lo que está ocurriendo con ese informe hablaremos con el sector

este gobierno a pesar en el hipotético caso de que ese informe sea positivo y conllevara la posible implantación de una tasa mal llamada tasa impuesto si el sector no está de acuerdo nunca lo vamos a implantar luego siempre de la mano del sector

también en este caso pero que quede claro elaboraremos un informe que nos permitirá conocer cuál ha sido la implicación en cataluña

en ningún caso lo implantaremos si el sector no está de acuerdo o contra el sector también me comenta qué haremos con gipuzkoa

entiendo que si la portavoz ha dicho que todavía está muy verde no sabe de quién es la competencia

luego prefiero ni pensar en ese caso y desde luego lo único que he hablado yo de recaudación es que en ningún caso

ya lo han impuesto con afanes recaudatorios a partir de ahí creo que el debate no era

simplemente lo que le he dicho es que este gobierno no tiene ningún afán recaudatorio y que este no es el objetivo del análisis

a todas luces en todos los ambientes pero no descarto que sigamos hablando me temo porque todavía alguna cosa tendré que aclarar seguramente reitero nuestra voluntad de trabajar siempre de la mano del sector turístico y hostelero en este ámbito y conoceremos muy de cerca

recientemente podíamos leer en prensa el país vasco toma como modelo las instalaciones ganaderas de salamanca y tengo que decirle señora consejera que desde el grupo popular

porque parece demostrar cierta inquietud en el departamento por buscar y explorar modelos de gestión de explotaciones ganaderas con rentabilidad y su posible aplicación en nuestra comunidad autónoma es por eso señora consejera que

saber cuál ha sido el objetivo concreto y las conclusiones de la visita realizada

eskerrik asko presidente andrea bueno como es de sobra conocido

sobre todo en el sector agroganadero la escalada de precios que está experimentando el mercado en materias primas cereales sobre todo en este caso desde el año dos mil diez en adelante y sobre todo dos mil diez dos mil once hace que los sectores consumidores intensivos en este tipo de cereales

muy crítica uno de los subsectores además más castigados es el del vacuno de carne

el modelo más extendido en euskadi actualmente se basa en una alimentación como sin duda su señoría conoce en base a pienso y paja y hace que la rentabilidad del proceso esté muy ligada a la situación del mercado de este tipo de materias primas por tanto es obligación de este gobierno buscar alternativas a la situación crítica del sector en este sentido

y en la dirección de agricultura y ganadería se están analizando distintas alternativas y se tuvo conocimiento de una experiencia pionera

que había apostado por un sistema de alimentación un tanto diferente

al de pienso y paja y que era un sistema de alimentación

en forraje en su modalidad que se llama que consiste en utilizar

fuente de alimentación principal y además acompañarlo de un porcentaje de pienso como complemento es decir bajaríamos la cantidad de pienso y por tanto el precio de alimentación es un sistema novedoso en vacuno de carne a pesar de que en vacuno de leche ya se había utilizado y puede presentar

precios además lo que se valoró era

desarrollan una mejor rumia y por tanto menos problemas sanitarios

y evidentemente el propio forraje es más económico y se decidió realizar una visita

el director de agricultura y ganadería asistió con un grupo de ganaderos además a ávila con objeto de analizar esta situación se realizaron

para analizar cómo se subastaban los animales y

después se fueron a alba de tormes y se visitó una cooperativa que dispone del producto mencionado y se observó cómo se utilizaba

y por último se visitó ávila que es de donde procedía la información inicial y se visitó un cebadero comunitario

las conclusiones obtenidas a priori al menos son muy positivas y lo que pretendemos llevar a cabo es una experiencia piloto para analizar después su posible implantación

como le decía señora consejera nos agrada que realmente se estén trabajando en el sector ganadero de carne sector que desde como decía usted hace unos cuantos años se está en una situación de crisis por la carestía principalmente de los

adolece de otros problemas como es la falta de renovación generacional que este es otro problema importante y que teniendo capacidad de aumentar la producción porque terreno nos sobra y puesto que producimos un treinta por ciento

también tenemos capacidad de crecimiento y que entendemos que eso también haría un sector ganadero mucho más potente con

por lo tanto este es un área importante conocemos esas explotaciones conocemos a los ganaderos que están interesados y que probablemente

entre otras cosas parte de su explotación está en mi pueblo por lo tanto los conozco perfectamente pero es que ellos mismos que son personas inquietas a pesar

por seguir trabajando en este sector creo que hay que

y son conocedores de la realidad que hay en españa y en otros países europeos donde casualmente se consigue rentabilidad en las explotaciones ganaderas y

eso no lo conseguimos entre otras cosas porque seguimos con métodos de hace más de veinte años con estructuras

el sector está cambiando y nosotros aquí no cambiamos por lo tanto me alegra que sigan en esa dirección y desde luego desde nuestro grupo

se atienda al sector ganadero y no hemos tenido respuesta por lo tanto animarles a que sigan
trabajando en esa dirección eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko

baina betiere sektorearekin beraz no tenga la menor duda señora lópez de ocariz que todo aquello que vayamos a implantar y a poner en marcha

de la mano de esos ganaderos y procuraremos que también este sector sea un sector productivo y que acompañe al desarrollo económico del país eskerrik asko

ateratzen diren legeak eta hain zuzen ere hau hemendik ateratako legea da quiero comentarle que el órgano competente en materia de formación agraria y náutico pesquera ha venido siendo zuk diozun bezala desde la creación del gobierno vasco en el ochenta y uno

el decreto cinco barra dos mil doce de veinticuatro de febrero modificaba tales funciones y áreas de actuación de tal manera que dentro de las competencias del departamento de agricultura y pesca desapareció

y fue sustituida por la de promoción de la capacitación profesional

esto fue así la situación actual creada por el decreto que usted menciona

hace que la competencia sobre formación agraria y náutico pesquera resida en el departamento competente es decir en el de desarrollo económico y competitividad del que cuelga toda la política agraria y pesquera

porque este marco legal y competencial está fijado por la ley diecisiete barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre donde dice que precisamente esto tiene que estar ligada a la política agraria luego se lo leeré

en dos mil ocho efectivamente la competencia agraria se había realizado mediante distintos decretos o decretos de áreas y de estructura

el artículo setenta de la ley dice lo siguiente el departamento de administración general de la comunidad autónoma del país vasco competente en materia agraria en colaboración

competente en materia de educación impulsará fomentará y desarrollará los programas de formación no universitaria en materia agraria y alimentaria

y se desarrollará directamente por el citado departamento es decir por el competente en materia agraria o por otras entidades previo acuerdo del consejo de gobierno la oferta formativa ligada a estos ámbitos se diseñara en coherencia con la contemplada en el sistema educativo vasco beraz

koordinazioa hezkuntzarekin konpetentea nekazaritza lankidetzan hezkuntzarekin por tanto lo que va a hacer este gobierno no es otra cosa que cumplir la ley cumplir la ley que emana de este parlamento de ningún otro sitio

en el ámbito competencial precisamente es potestad del gobierno vasco la creación supresión y modificación de departamentos y en este caso se han

esta competencia queda en el departamento que dirijo la decisión del traspaso de las escuelas al departamento de desarrollo económico y competitividad responde precisamente a el cumplimiento de esa ley a ninguna otra cosa y de esa manera entendemos además que se garantiza la formación y el futuro del sector agrario

propuesta para materializar el traspaso de las escuelas agrarias y náutico pesqueras al departamento de desarrollo económico

en el pleno de ayer este parlamento pidió por unanimidad al gobierno que dé los pasos necesarios para la erradicación de las prácticas contractuales abusivas el caso que nos ocupa en las últimas semanas en esta cámara que son los ahorros

es una fórmula legal que contempla el artículo ocho de la ley de cooperativas en vigor

nos han solicitado modificar esta ley para evitar males futuros como el que ahora pretendemos dar solución y como hemos tenido oportunidad de decir reiteradamente los socialistas en esta cámara nuestras iniciativas están orientadas a resolver problemas presentes y futuros de los ciudadanos

desde la ley original de mil novecientos noventa y tres y recuperada en la reforma del dos mil hoy sabemos sus efectos lo que queremos saber ahora

si va a proponer a esta cámara una modificación de la ley de cooperativas que elimine o regule las participaciones subordinadas

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi el gobierno vasco todavía como es conocido no ha aprobado su programa legislativo

promover modificaciones legislativas en relación con las cooperativas pero a fecha de hoy no tenemos previsto ningún cambio en materia de participaciones subordinadas su regulación se incorporó a la normativa legal en el año dos mil por la ley

las financiaciones subordinadas cumplen una función como aportación financiera

otra cosa diferente es cómo se ofrecen y se colocan en el mercado eskerrik asko aburto jauna

hoy parece que se empieza a recuperar la senda

corregir esta ley evitaría que ocurriese eso que ha dicho usted que nuevos afectados sobre todo

caer en esta cuestión pero evitará también dificultades futuras a las cooperativas porque seguirán encontrándose con problemas de financiación los que en adelante añadirá altas dosis de desconfianza pero le adelante que nuestro grupo sí es sensible traerá ya la propuesta legal para eliminar esa previsión los socialistas vascos nos opusimos expresamente a este artículo en el debate de la ley del año dos mil literalmente dijo nuestra portavoz en ese debate con este artículo desde nuestro punto de vista se da un paso de alto riesgo hacía la desnaturalización de la figura cooperativa

de la misma las aportaciones de los no socios con lo que se aproxima de manera excesiva y peligrosamente a las entidades de capital

siquiera de las cooperativas sino de los bancos y ese riesgo se ha transformado en daño real para clientes que efectivamente asumen

que no pueden ser igual tener acciones en un banco que tener participaciones en una cooperativa ahora insisto lo que corresponde es corregir ese error y no pretendo entrar en más profundidades sobre el empeño

en empresas que tienen un concepto distinto del común de las sociedades mercantiles esta previsión fue equivocada y nos corresponde enmendarlo es fácil y es rápido solo se necesita voluntad

respeto a esta cámara y lo que hacemos es cumplir la ley ayer mismo

y solamente el grupo socialista pretendía la modificación de la ley el resto de los grupos no opinaban de esa manera no obstante si en el futuro llegamos a acuerdos y a consensos

mire la finalidad de la ley en este caso es allegar recursos financieros a las cooperativas recursos con la consideración de capital social para ello deben de tener la misma permanencia que el citado capital social se prevé no obstante su reembolso con garantía equivalentes a las participaciones de las sociedades de capital

explicada en la propia exposición de motivos se regula el régimen dice entre comillas de las denominadas aportaciones financieras subordinadas para allegar financiación fundamentalmente externa sin obviar la interna

considerándose capital social sujetas a las condiciones que se establezcan la propuesta

y como he dicho se aprobó por esta cámara con mayoría suficiente como he dicho cumplen una función cosa diferente es cómo se colocan en el mercado

euskadi fue la primera en regular la financiación subordinada pero no la única así esta regulación también se introduce en la ley estatal de cooperativas en su artículo cincuenta y tres

con el nombre de participaciones especiales en todo caso este tipo de participaciones están controladas por la comisión nacional del mercado de valores y no quisiera terminar esta intervención sin mostrar mi solidaridad mi cariño y mi respeto hacia belén greaves

una situación injusta a la cual creo que ha respondido con unas dosis de generosidad que no son habituales

buenos días consejero esta mañana se ha leído aquí la respuesta que dio usted el día veinticuatro de mayo a la interpelación sobre

su respuesta me pareció sensata y franca pero ya ve

y algo de esto sabemos los socialistas lo que pasa es que en su caso es más grave y más penoso por lo menos pensamos y

del grupo parlamentario que en tiempo de fotomatón

al gobierno mi propósito aquí no es debatir sobre este asunto porque tiempo habrá para ello y además el grupo parlamentario

ya dijo que iba a dedicarle solo un minuto por lo tanto no es ese mi propósito

sabe usted que en estas fechas se suele preparar los calendarios laborales para el año siguiente

sobre este periodo porque luego vienen diputaciones vienen ayuntamientos y claro la propia proposición de ley que hace el grupo parlamentario nacionalista

por lo tanto nos parece que esa es una fecha un poco lejana para saber en orden a colegios calendarios laborales saber

preparar el calendario laboral para el próximo ejercicio

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok señor itxaso yo le agradezco de verdad su preocupación hacia la figura de este consejero

respaldado por mi grupo parlamentario y se lo digo con la misma franqueza que se lo dije el otro día lo que fue mi intervención en esta tribuna de todas formas cualquier

seguir hablando cuantas veces sea necesario del veinticinco de octubre

que va a ser con su permiso a lo que me voy a ceñir el calendario oficial de fiestas laborales para el dos mil catorce está previsto que sea aprobado a lo largo de este mes en el consejo de gobierno

y quedan de recibir algunos informes preceptivos incluso informes de otros organismos para su aprobación y su posterior publicación

estimamos que pudiera producirse entorno a la primera quincena del mes de julio eskerrik asko aburto jauna

mucho más que añadir en todo caso esperar que efectivamente los plazos que

vayan a cumplir y se pueda dar curso efectivamente a todas las cuestiones que se derivan de este calendario laboral

de este tipo de debates que son muy legítimos y seguramente pertinentes pero que

al albur de las circunstancias y sin concretar

tienen previsto esperamos que se cumplan los plazos nada más y muchas gracias

sí la tramitación del calendario laboral una vez resulten definidas las festividades va a incluir

que las festividades que van a incluir en el mismo dentro del ámbito de competencia es un decreto que no reviste en sí una especial complejidad pero sí resulta

tramitación que lleva un tiempo habida cuenta de que intervienen como usted mismo ha reconocido diversos organismos e instancias concretamente además de los elementos internos

de las diputaciones forales así como en virtud del acuerdo con la santa sede

habitualmente se inicia en la dirección de trabajo y seguridad social del departamento a principios de año en este ejercicio se ha demorado el inicio del procedimiento

debido a que el gobierno del estado viene anunciando tanto en comunicaciones de la dirección general de empleo y del ministerio de empleo y seguridad social a las propias comunidades autónomas a través de los medios de comunicación su intención de introducir modificaciones en el estatuto de los trabajadores que van a afectar al calendario laboral de fiestas del estado y que por lo tanto pudieran tener que ser contempladas en nuestro calendario laboral

transcurre el tiempo sin que esas modificaciones se concreten ha sido decisión de este gobierno iniciar la tramitación del calendario

laboral para el año dos mil catorce de acuerdo con las normas actualmente vigentes ya que es un elemento necesario

de las relaciones laborales en las empresas como para otras instancias que se ven afectadas por dicho calendario laboral como usted bien decía ámbito educativo por ejemplo

similares si finalmente se produjera la modificación del estatuto de los trabajadores y la derogación de las normas específicas de regulación de esta materia que he expuesto con anterioridad el calendario laboral que se haya aprobado por esta comunidad

habrá de ser adecuado en los extremos que correspondan

igualmente igualmente si esta cámara tomara otras decisiones hay que recordar que el principio de jerarquía normativa hace que el decreto tenga que ser

por lo tanto en ese caso también el departamento adecuaría

para este gobierno vasco desde este departamento de seguridad y desde la dirección de tráfico todo lo relacionado con la seguridad de los usuarios y usuarias de nuestras carreteras

la seguridad de los automovilistas de los motoristas y de ciclistas y también de los peatones está totalmente interrelacionada y los ciclistas son sin duda un eslabón débil del que nos tenemos que ocupar para garantizar su seguridad y para lograr al mismo tiempo que se conciencien de los riesgos que corren estamos trabajando con estos dos objetivos y para ello la dirección de tráfico

parlamentario que le pedía por un lado confeccionar la guía que marque las pautas de seguridad de los ciclistas

y difundir esos contenidos de la guía mediante una campaña de sensibilización pues bien señora ubera la guía ya está elaborada la dirección de tráfico ha dirigido un grupo de trabajo multidisciplinar se consultó a las federaciones de ciclistas

territoriales y con sus aportaciones y el trabajo de los expertos que han formado parte de este grupo

hemos confeccionado la guía que presentaremos en breve el objetivo es buscar siempre la seguridad de los ciclistas con una filosofía clara de seguridad en carretera

basada lógicamente en la precaución y en el respeto mutuo eskerrik asko

ni esporádico porque ya desde la dirección de tráfico a lo largo de este mismo año se han

colocación de mensajes con esa misma filosofía en los paneles móviles

vías secundarias efectivamente como usted dice y somos conscientes de que los ciclistas y las personas que utilizan la carretera para hacer deporte fundamentalmente son colectivos vulnerables

no solamente para mejorar las vías y para prevenir sino también de concienciación de educación de unos y otros tanto de los

conductores es verdad en este año llevamos un total de sesenta y dos accidentes de tráfico con una implicación de usuarios de bicicletas y desgraciadamente

tres ciclistas estos datos lógicamente nos obligan a intensificar las campañas de concienciación de sensibilización como dice usted de educación este mismo mes como le he dicho presentaremos la guía a la que he hecho alusión anteriormente

es una manera de reforzar lo que ya venimos como ya le he dicho haciendo mediante esos consejos radiofónicos y paneles móviles

trabajar todos los aspectos relacionados con la seguridad vial de los usuarios teniendo en cuenta que en la carretera todos podemos ser amenaza o víctima eskerrik asko

lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta lehendakari consejera señora consejera

sobre la redacción y tramitación de los expedientes para designación de zonas

doy por hecho que es suficientemente conocida la directiva europea de la conservación de los hábitat naturales de la flora

conocida red natura dos mil entiendo también que es conocido por todos nosotros como nuestra comunidad autónoma declaró seis zonas de especial protección para las

propuesta que se elevó a la comisión europea y que esta aprobó en varias fases dando seis años de plazo desde la aprobación para la elaboración de los planes e instrumentos de gestión para la designación de las zonas especiales de conservación zec plazos por cierto superados ampliamente

hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los documentos elaborados por la dirección de biodiversidad del gobierno vasco de medidas de conservación de los espacios de la red natura dos mil especialmente de álava especialmente la sierra de entzia

algunos de ellos han expuesto en talleres de participación ciudadana y sorprenden varios aspectos tanto jurídicos como técnico ambientales donde desde el grupo popular entendemos que no se respetan las competencias que en materia de montes y de gestión de espacios naturales protegidos corresponden o recaen legalmente en las diputaciones forales otro lado no comprendemos los diagnósticos desacertados de la problemática ambiental de los espacios y la ausencia de medidas de conservación eficaces que permitan garantizar

si nos fijamos en la distribución de competencias vigentes en la comunidad autónoma vasca en materias de espacios naturales protegidos

de conservación elaborados como decía por la dirección de biodiversidad no señalan un órgano ambiental competente y responsable de la gestión de los zec de manera que no se puede saber quién es el órgano de administración responsable en la ejecución de las medidas de conservación y a su vez

por parte de otros agentes que intervienen en estos espacios protegidos

mientras que la gestión de estos espacios es competencia de las diputaciones forales todo ello enmarcado en la necesaria coordinación interinstitucional entre administraciones

el artículo siete de la ley de relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma del país vasco y los órganos forales de sus territorios históricos

y el artículo veintiséis de esta misma ley que establece como función del órgano gestor de un espacio natural protegido en este caso velar por el cumplimiento de las normas que para su protección se prevean en el plan de ordenación de recursos naturales o en su caso en la norma de su declaración emitiendo los informes y autorizaciones pertinentes como se puede deducir en esta tramitación existen claros ejemplos de incumplimiento de la legislación que nos afecta

en la elaboración de estos documentos no se designa

siguiendo con la observación de los documentos elaborados por la dirección de biodiversidad podemos ver que se plantea introducir en los montes de utilidad pública

vulnerándose nuevamente las competencias exclusivas de las diputaciones forales en esta materia en álava por ejemplo

y que desde hace más de un siglo vienen ordenándose y gestionándose históricamente por la diputación por ejemplo en el

es de utilidad pública y esta gestión sostenible ha sido determinante para que ahora

naturalística europea los montes de utilidad pública se declaran como tales para satisfacer necesidades de interés general al desempeñar funciones de carácter protector social o ambiental podríamos citar la regeneración y conservación de los suelos evitar la erosión captación protección y conservación de los recursos hídricos protección de flora y fauna mantenimiento de los equilibrios ecológicos preservación del paisaje y diversidad genética así como la mejora de las condiciones socio económicas

los principios de gestión que se aplican se adecuan a los objetivos de conservación de la red natura dos mil y se encuentran recogidos en sus correspondientes normas forales el entendimiento entre usuarios y titulares de los terrenos con la diputación como administración competente ha permitido que los montes de utilidad pública de álava

fabuloso introducir una nueva administración gestora tal y como se desprende de los documentos observados

un error porque solo generaría nuevas e injustificadas medidas reguladoras y gestoras y condiciones a los propietarios y usuarios dando lugar a conflictos innecesarios que afectarían muy negativamente a la protección de los espacios y de las especies

es desfavorable y como medidas de conservación se propone casi exclusivamente prohibir limitar

que históricamente vienen desarrollándose en este espacio y que en gran medida han permitido que lleguen al día de hoy en estupendo estado de conservación

de usos no tradicionales o externos me refiero a recalificaciones o reclasificaciones urbanísticas de suelo rústico

infraestructuras viarias etcétera es sorprendente que se limite y condicione las actividades y usos históricos que han originado

y se ignoren planes y proyectos que pueden suponer una clara amenaza para estos espacios

por elegir un ámbito fluvial se evidencian fallos claros en el diagnóstico para nada se habla de medidas para solucionar el problema de calidad y estado ecológico de las aguas a pesar de que este es el gran problema del río zadorra

de depuración o a posibles excavaciones en el entorno o en los márgenes por otra parte se plantea una desproporcionada

y lo que también es sorprendente es que gran parte de la financiación de la red natura dos mil descanse en el plan de desarrollo rural sostenible

forestal o de la pesca nada tiene que ver con la financiación

los objetivos son totalmente distintos igual que es distinto el ámbito de aplicación lo que dice el artículo ocho de la directiva europea de conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres es que se debe presentar una estimación económica

a los efectos de definir un sistema de cofinanciación comunitaria que permita cumplir con las obligaciones de protección de los espacios y especies

el pdrs debe de participar

en los documentos que hemos observado señora consejera he tenido la oportunidad de participar en dos talleres de información pública

hubo un problema importante había mucho desacuerdo creo que

mandamos un escrito pidiendo una moratoria porque no comprendíamos aquel documento

un informe de la empresa que está gestionando estos talleres nosotros desde el grupo popular queremos saber cuál es el propósito del gobierno en el futuro de estos documentos de los zec y si es propósito del gobierno

se desprende de los documentos observados creemos que se están usurpando unas competencias importantes de las diputaciones forales y es lo que le preguntamos al gobierno

efectivamente como usted bien ha explicado el proceso de conversión de los lugares de interés comunitario conocidos como

conlleva mucho trabajo la elaboración de documentos técnicos y sobre todo mucha concertación

como con las administraciones implicadas ese proceso como usted también nos ha recordado

de los lics propuestos desde la comunidad autónoma del país vasco de cincuenta y dos lugares

de especial protección para la aves a partir de ahí se inició un proceso un largo proceso de conversión en zecs que todavía está abierto por lo tanto está en marcha y todavía sobre todo en la parte alavesa

está pendiente de cerrar y le avanzo aunque creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión que en el calendario que manejamos es que tengamos las declaraciones

tal y como estamos trabajando en cuanto a su preocupación de los temas competenciales decirle que la forma de trabajar con las diputaciones y con otras administraciones

desde el gobierno vasco se remitió un documento de un acuerdo un documento

adoptados en una reunión del gobierno con las diputaciones y se establecían un poco las líneas de trabajo a seguir en cuanto a las medidas de conservación que se estaban trabajando para los zep estas premisas eran que las medidas de conservación debían ser pragmáticas y realistas

el marco y el reparto competencial esto insisto fue enviado o aceptado por todas las partes en abril del dos mil once bien a partir de diciembre del

cuando yo retomo este tema como usted bien sabe

las administraciones competentes en la posterior gestión de los espacios que efectivamente serían las

otros entes gestores como puede ser la agencia vasco del agua por ejemplo e iniciamos una línea de trabajo

más cercana diría yo con las diputaciones forales y en concreto le puede decir que desde enero del dos mil trece entre el gobierno vasco y las diputaciones ha habido ya varias reuniones por ejemplo el veintidós de marzo con la diputación de álava

de trabajo y de elaboración más allá de las reuniones más protocolarias entre diputados y consejera o viceconsejeros

y veintinueve de mayo con las tres diputaciones en la sede del gobierno vasco en el que se estableció de común acuerdo un procedimiento de trabajo para la

en la que usted estaba incidiendo en mayo se han adjudicado tenemos en este momento declaradas

por recordarlo tenemos ya aprobadas definitivamente diecinueve zonas perdón aprobadas el dieciséis de octubre del dos mil doce diecinueve zonas

ahora recientemente el otro día en el consejo de gobierno de cuatro de junio hemos aprobado otras diez y las que nos faltan precisamente en su mayor parte son las alavesas porque por la

y son las que en este momento estamos impulsando para ello hemos adjudicado los contratos a varias empresas para la realización de los trabajos técnicos para realizar estas quince

y han sido adjudicadas en mayo acabaremos los trabajos para finales de dos mil catorce

uno de los objetivos es integrar desde el primer momento las demandas de las diputaciones forales y por eso hemos modificado el procedimiento de trabajo

en aplicación de la legislación vigente teniendo en cuenta que serían las administraciones gestoras de los espacios y les hemos ofrecido la posibilidad de formar equipos mixtos con el gobierno y con las consultoras para la elaboración conjunta

con la función de construir los documentos conjuntamente desde el inicio de los procesos en la dinámica básica contempla la utilización conjunta de una plataforma web para el intercambio de puesta en común de información documentos de trabajo materiales reuniones periódicas

dependiendo de las necesidades y la presencia conjunta de las administraciones en todos los procesos de participación social y la cooperación en el procedimiento de la tramitación administrativa por tanto decirle concretamente yendo a su pregunta o su última pregunta concreta

tiene propósito de modificar las competencias respecto a la gestión de los espacios pues decirle claramente que no este departamento es absolutamente respetuoso con las competencias que establecen en nuestras leyes en las diferentes administraciones y estamos trabajando para satisfacer y mejorar en los procesos de declaración de los espacios
alineado con esa premisa de respeto institucional en primer lugar eskerrik akso eskerrik asko oregi

sí señora consejera yo le quiero creer cuando me dice usted que no pero es que si yo buceo por la página de su departamento y entro en

y pone institución y órgano responsable de la gestión gobierno vasco si voy al lic del zadorra pasa lo mismo

gobierno vasco si voy a lic de las lagunas de la guardia pues me pasa lo mismo

entendiendo su respuesta me gustaría que también las páginas de su departamento se ajuste a la realidad yo entiendo que y aquí lo podemos ver cómo la lth

y ha suscitado desde su elaboración distintas reacciones

de conocimiento muchos no conocíamos o no conocían

entiendo la fase de rebeldía que también la hubo desde las administraciones pero ya con una lth de treinta años adulta como todos nosotros supuestamente adultos creo que es un elemento a respetar y a nosotros

documentos donde efectivamente se vulnera una vez más la lth y de verdad

aunque algunos están en esta cámara gracias

de este gobierno que no la tengan en consideración

debemos de llevar un orden y un respeto a las administraciones competentes y no estar suscitando debates permanentemente en torno

la ley de relaciones entre instituciones gobierno vasco y diputaciones forales yo creo que es bastante clara y a día de hoy todos sabemos perfectamente hasta dónde llegan los límites en cada

y debemos ser muy respetuosos porque suscita

y perdemos mucho tiempo por lo tanto yo lo que le pido es que corrija estos errores que se dan desde nuestro punto de vista errores que se dan en su página

las aportaciones de las diputaciones forales o órganos gestores

y que también tiene su historia como en otras zonas puede haber patronatos de parques naturales o otros órganos gestores que vienen desarrollando su actividad y habrá que pensar qué elemento es el primordial para no solapar medidas de uno y otro ente que participa por lo tanto yo creo que

pero es también importante clarificar exactamente quién va a ser el gestor y qué medidas corresponde a cada cual porque sino la gestión va a ser complicada y

es complicado también por lo tanto creo que estamos en la fase de corregir errores

hacer una política transparente con todos los agentes que intervienen en la fase y la pregunta que me queda es si estos

si tienen pensado qué hacer por ejemplo con este

río zadorra se va a modificar el documento para ponerlo

bai bueno como he dicho

es en el mes de mayo en este pasado mes de mayo se

cuando hemos tenido la primera reunión inicial

integrados por el gobierno por las diputaciones forales y esas empresas adjudicatarias y en particular con el tema de álava para empezar a rehacer todos esos documentos si hay algún error en la página web no

de que lo corregiremos y por otra parte también quería poner de manifiesto que

y que efectivamente son los que han hecho esa forma de trabajar y esa cultura de nuestros ciudadanos y ciudadanas

legado natural y cultural en nuestro entorno por tanto somos absolutamente respetuosos con todo eso

la agencia del agua he puesto puntos suspensivos por supuesto la parzonería

que participan en la gestión de estos espacios creemos que son no solamente

por tanto esa es la línea de trabajo que estamos manteniendo si hay alguna discrepancia con alguno de nuestros documentos en las páginas web son los trabajos que hemos puesto ahora mismo hemos arrancado al día la puesta en marcha de todo eso y efectivamente vamos a de esos grupos de trabajo conjuntos con las diputaciones y con el resto de entes

ahora la sabiduría suprema como para saber cómo van a acabar los documentos porque para eso están los grupos de trabajo y espero que den sus frutos tenemos unos calendarios bien medidos creo tampoco queremos hacernos trampas y por eso estamos diciendo con absoluta responsabilidad que

una vez hecho todos esos procesos información pública trabajo conjunto cuando seamos capaces de tener todos los documentos eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako

sí gracias señora presidenta para concluir la sesión de la mañana o pleno de control bueno pues es un asunto conocido el seguimiento seguimiento del asunto del puerto seco del puerto de bilbao y sus repercusiones en lo que hemos calificado en una reciente comparecencia pues todos los grupos parlamentarios como un asunto de país hace algo así como cuatro meses un poco menos la señora consejera afirmó con claridad en respuesta a una pregunta parlamentaria que

en un nodo logístico para el transporte internacional de mercancías ya que hablamos en concreto del puerto de bilbao decir que estamos empeñados en impulsar la variante sur ferroviaria y una red de plataformas logísticas ya construidas dentro del mismo territorio

esto ha seguido hemos tenido y hemos recibido informaciones periodísticas

en su momento hemos asistido a la comparecencia

de la autoridad portuaria de bilbao el señor atutxa en una comparecencia pues en un momento importante

y seguir recabando del gobierno información porque desde aquella comparecencia suya de hace

importancia la información del gobierno es relevante el gobierno está también en el consejo de administración del puerto de bilbao se toman decisiones en esa institución en esta materia la posición del gobierno condiciona facilita la adopción de decisiones por parte del puerto de bilbao y la autoridad portuaria y es un momento estratégico estamos en un momento estratégico

pues pueda estar también en el país vasco y pueda estar también pues seguramente y en ese sentido pues conocer la posición a día de hoy del gobierno vasco

barrio jauna bueno efectivamente como ya dije en la anterior pregunta que usted me hizo aquí

nosotros estamos impulsando la posibilidad de que arasur sea

una de las posibilidades o uno de los puertos secos que tiene el puerto de bilbao

una más también y estamos trabajando totalmente implicados y totalmente en conjunto con la autoridad portuaria de bilbao

su pregunta me hacía referencia a informaciones periodísticas bueno con todo el respeto a los medios de comunicación

y el esfuerzo que está haciendo la autoridad portuaria para

los problemas o las dificultades técnicas que pueda tener la entrada

la puesta en el mapa de arasur no es en absoluto responsabilidad exclusiva

está implicada está trabajando y está en relación tanto con arasur como con las diferentes administraciones que conformamos el consejo de administración

esto dé sus frutos pero hay otras administraciones como usted bien sabe que están absolutamente implicadas también ahí y que nos gustaría ver que

el gobierno español como la diputación foral de álava eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

gracias señora presidenta gracias señora consejera por sus explicaciones que parece que mantienen el ritmo de lo que hace cuatro meses nos habló nosotros estamos en el parlamento vasco y el control que nosotros podemos hacer aquí es al gobierno vasco y eso es lo que hacemos y pedirle implicación al gobierno vasco

y ahí estarán otras administraciones pero efectivamente nosotros y a mí en concreto me toca

la labor del gobierno vasco y por eso yo le hago esta pregunta y no quepa duda que

momento estratégico en relación con decisiones muy importantes que tomar

y en relación con que el país vasco se beneficie de ese movimiento económico importante

que va a desplegar esa nueva infraestructura ya diseñada ya proyectada necesaria para el superpuerto de bilbao en ese sentido

lo que quiero preguntarle porque siguiendo el hilo

aquí el señor atutxa el señor presidente de la autoridad portuaria declaró que

a mí me gustaría saber si se le ha pedido ya al gobierno vasco involucrarse

va a participar si ha habido ya contactos con la autoridad portuaria para entender que todas estas cuestiones no son temas fáciles sino que son temas complejos y si el gobierno vasco va a participar

en qué medida o de qué manera significativa muchísimas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio sí vamos a participar no es que vayamos a participar estamos participando estamos desde el minuto cero trabajando con la autoridad portuaria de bilbao

nosotros también en los lugares donde estamos con las otras administraciones que he citado antes también nosotros

de todo ese espacio de arasur por tanto reiterarle que efectivamente nuestra implicación es total apostando por el buen desarrollo de arasur

compartimos esta reflexión que hacen desde la autoridad portuaria de bilbao de que son compatibles

y en arasur hay algunas cuestiones que tenemos que resolver como por ejemplo la conexión ferroviaria y algunas otras cuestiones y es en lo que estamos trabajando